gracias presidenta y buenos días a todos lehendakari señores y señoras consejeras esta pregunta como es lógico no le sonará nueva

hablar de este tema y les he preguntado a los diferentes consejeros afectados por la forma en la que van a gestionarlo y la pregunta es directa cuándo van a atender a quienes no pueden pagar sus facturas de luz o gas

es una pregunta sencilla para la que creemos que la fecha

es responder a una realidad que primero ustedes se negaron a aceptar

y debieron asumirlo ante la evidencia señalada por todos los informes incluso por los suyos propios la evidencia de que a pesar de que contemos con el mejor modelo de protección social hay grietas que debemos taponar en los últimos presupuestos los socialistas introdujimos una partida específica doscientos mil euros

de convenio con las organizaciones dispuestas a colaborar en la tarea estamos en octubre señor lehendakari cuándo va a usted a cumplir el mandato parlamentario incluso su propio compromiso

beraien argi gas edo uraren horniketak con fecha de mayo dos mil quince el día doce elaboramos un borrador de convenio de colaboración entre

donde se recogían dos líneas de trabajo por un lado los cheques y suministros y por otro lado los acompañamientos y la formación con ello pretendíamos dar respuesta tanto al primer mandato como a la segunda parte del mandato parlamentario el gobierno conoce la actividad las propuestas que viene desarrollando la cruz roja en este ámbito

para el desarrollo de este tipo de prestaciones y a las personas y familias que por diversas circunstancias presentan problemáticas diversas como esta de pobreza energética y como las otras de refugiado que estamos viendo a lo largo de estas semanas la tramitación del convenio es cierto que

no por responsabilidad nuestra sino debido a la emisión de un mero apoderamiento que tenía que otorgar ante notario

y que no se ha podido hacer efectivo hasta mediados de julio pero

puedo decir en esta cámara y en este momento que próximo martes

procederemos a la aprobación de la subvención por el consejo de gobierno de esta partida de pobreza energética y sobre la segunda proposición no de ley que se nos instó a mediar con las empresas energéticas para que se posibilitase la renegociación de la deuda de las familias

y para que si existían razones económicas sobrevenidas pudiéramos actuar al respecto nos pusimos en contacto con todas las empresas más importantes del sector

suministradoras del sector a resultas de la cual hemos mantenido reuniones con las más importantes con las que se han puesto en contacto con nosotros y dispuestas

a ver señor consejero esa es una iniciativa que es

primero el grupo parlamentario socialista trae el tema durante más de un año en el que ustedes negaron la realidad segundo conseguimos negociar con ustedes en el presupuesto una partida presupuestaria tres meses

en marzo ponemos la solución sobre la mesa que es la firma del convenio con el tercer sector

qué entidades podían estar interesadas por la forma que tienen de ayudar en este tipo de situaciones tenían el agente que estaba dispuesto a hacerlo tenían la partida presupuestaria

definen a cruz roja como el sujeto estratégico para llevar esto a cabo y dice que es que claro hasta mediados de julio

es que la realidad es diferente depende quién la cuente y como en todo hay dos versiones ustedes han pedido muchos muchos pasos burocráticos para poder firmar este convenio a una entidad que con ustedes han firmado muchísimos convenios porque es una importantísima colaboradora con los gobiernos y que está encima de lo que tiene que ver con este tipo de ayudas la realidad es que estamos en octubre ustedes ya estarán trabajando

y mire que tiempo tenemos está el invierno sobre la mesa y las entidades están adelantando un dinero que ustedes se comprometieron en dar

ustedes tendrán que plantear medidas o herramientas para que esto no vuelva a suceder

también tenía un punto de futuro porque en realidad lo que se pretendía era que el tercer sector estuviera involucrado fundamentalmente en este ejercicio presupuestario por temas de tiempo y de estrategia no daba tiempo a que el gobierno pudiera poner en marcha otro tipo de herramientas pero les forzaba a ustedes o les obligaba a pensar qué iban a hacer en el ejercicio presupuestario siguiente y no sé porque me da que esa parte nada han tardado casi diez meses en firmar el convenio o sea un compromiso de doscientos mil euros que ustedes sabían desde el principio que no iba a solucionar el problema

el gobierno entendía que tenía que hacer para decir que le interesaba algo que llevaban negando durante un año entonces hombre me dice que lo va a firmar el martes seis pues me alegro pero no sé que hubiera pasado desde el grupo socialista no hubiera presentado esta iniciativa
y si la señora idoia mendia no hubiera hablado de esto en el pleno de política general eskerrik asko rojo andrea

señora rojo en marzo distintas entidades

tuvimos que identificar a la cruz roja firmar un convenio usted sabe bien el partido socialista sabe muy bien que no es simple por los trámites administrativos que tiene en todo caso quiero destacar que el resultado de las reuniones que hemos tenido con las

han sido favorables a que se llegue a un acuerdo y que tenga el lugar la renovación de la deuda de las familias

o y gas se solicitará el restablecimiento del suministro en el caso de que hubiese estado suspendido por impago antes de recibir la comunicación de la cruz roja proporcionarán información detallada sobre todas las facturas pendientes de beneficiario que sean objeto de suspensión del suministro

a la cruz roja sobre distintos aspectos con la aprobación el próximo martes

efectivamente más tiempo del que todos hubiéramos deseado desde luego las partidas estarán ciertamente previstas para este invierno que todavía afortunadamente no nos ha llegado pero que estarán

etengabeko prestakuntzari buruz pastor jauna zurea da hitza sí señoría con su permiso para dar por formulada la pregunta

formulada la pregunta perdón lehendakari jauna

legebiltzarkideak egun on formulada la pregunta señor pastor

y enviados a lanbide para su tramitación la procedió a emitir los correspondientes informes positivos y el consejo de gobierno los aprobó

para la reforma urgente del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral ese mismo día

sobre el que se informaron los proyectos de convocatorias se había modificado sustancialmente por lo que se recomendaba rehacer los textos el día treinta y uno de julio lanbide remitió

dos nuevos textos para la emisión de los correspondientes informes el día

hace veintidós días se publicó en el boe la ley treinta barra dos mil quince por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral tras la publicación de la ley treinta barra dos mil quince el diez de septiembre

la lectura jurídica de los textos ya que este nuevo texto legal

un nuevo escenario jurídico para la comunidad autónoma del país vasco estamos en un proceso continuo de demora derivado de los continuos cambios que ha introducido en la legislación el gobierno central y el congreso de los diputados en ningún caso el retraso obedece a motivos económicos sino a aspectos legales que son insoslayables y que han ido alargando durante todo este proceso hasta el diez de septiembre

oso garrantzitsuak direlako en el día de ayer uno de octubre de dos mil quince

dos informes correspondientes a las dos convocatorias que estaban pendientes un informe positivo sobre la convocatoria directa a las empresas y un informe negativo sobre la convocatoria a centros de formación y para concluir con estos datos

al consejo de administración de lanbide la modificación de la convocatoria de los centros de formación para adaptarla al informe que nos ha emitido

no se ha debido a problemas presupuestarios sino a la inseguridad en la que nos hemos visto inmersos por el cambio de modelo jurídico la formación continua no se ha detenido por otro lado durante el presente año

están resueltas las convocatorias de hobetuz para esa formación etorkizunera begira gure

señor toña esta es la tercera vez en este año que mi grupo se interesa por el asunto de la formación continua para los trabajadores ocupados una cuestión que nos parece fundamental en un entorno de crisis y de cambio acelerado de los procesos de producción a principios de marzo le interpelé a usted por el retraso de su gobierno

que el patronato de hobetuz había dejado preparados ya en diciembre del año pasado expresé también la sospecha de que estaban durmiendo el asunto para dar tiempo a que el gobierno del pp aprobara la reforma que tenía anunciada en esa materia y así de paso ahorrarse

usted nos dijo que no había retraso alguno que se iban a dar los cursos previstos sí o sí y que el decreto de la convocatoria del dos mil quince lo aprobaría el gobierno el veinticuatro de marzo y sucedió lo que nos temíamos que el señor rajoy fue más diligente que ustedes y aprobó el real decreto de reforma de la formación continua antes que el gobierno vasco su convocatoria

y usted me dijo que no había más remedio que dejar sobre la mesa del consejo de gobierno la convocatoria

pero que su gobierno iba a convocar todos los cursos previstos y que era su voluntad preservar e impulsar la formación continua la cuestión es cuándo se va a hacer de verdad esto estamos en octubre han pasado seis meses desde entonces y alrededor de cincuenta mil vascos siguen esperando a acceder a una formación que les permita mejorar

porque el decreto de convocatoria del dos mil quince todavía no ha sido aprobado por su gobierno y el procedimiento de adjudicación como es normal y usted conoce perfectamente tarda su tiempo

pero probablemente ese embrollo se hubiera evitado si hubieran aprobado la convocatoria antes del veinte de marzo como yo les indiqué porque tiempo y advertencias este gobierno tuvo de sobra

que dos mil quince va a ser un año perdido para la formación continua en euskadi incluso para poner en peligro algunas empresas dedicadas a la formación que se están viendo en situaciones angustiosas ya en este momento sobre todo en el momento en que más se necesita la formación de los trabajadores y su gobierno señor toña no puede lavarse las manos porque ha sido protagonista principal

por incapacidad para gestionar por cálculo político porque les viene muy bien ahorrar el dinero no lo sé pero en todo caso a nosotros nos parece que los socialistas entendemos que la formación es algo muy importante fundamental para el progreso de la sociedad tanto en la etapa escolar

y a lo largo de la vida de las personas atendiendo a las propias urgencias

necesita de trabajadores perfectamente preparados sin embargo

ya conocía que la había mandado el informe sabía que se iba a mandar a lanbide pero en cualquier caso el año dos mil quince está a punto de terminar y la formación continua ha sido

y arrastras y a exigencias del grupo socialista porque si no tengo mis dudas siquiera de que los informes se hubieran evacuado en el tiempo en el que se ha hecho

le aseguro que todo esto en todo caso ha sido preparado por usted para hacerlo así y en mi caso para hacerlo de esta manera

quiere y tiene tanto interés como usted en hacer posible

interesante aunque pudiera parecer que no nos afecta a los vascos yo creo que sí nos afecta porque se trata de un asunto relacionado con la pedagogía democrática que todo representante público debe realizar en relación al cumplimiento

aproximadamente dos meses y medio usted expresó su rechazo a que se adopten medidas jurídicas traumáticas como la suspensión de la autonomía catalana abogando por el diálogo y la negociación bilateral para encauzar el debate sobre cataluña

de justicia rafael catalá quien dijo que el artículo ciento cincuenta y cinco de la constitución está plenamente en vigor y es posible

no nos ha sorprendido el contenido de las declaraciones del consejero al fin y al cabo ya sabemos que el nacionalismo vasco siempre ha mantenido un principio de solidaridad con otros nacionalismos

al incumplimiento de la legalidad vigente y en la defensa de sus intereses

que usted defina como traumáticas determinadas medidas jurídicas que están incorporadas en la propia constitución española señor erkoreka cumplir y hacer cumplir la ley es traumático los nacionalistas están por encima de la ley la legalidad vigente no les afecta acaso la ley no es igual para todos tampoco por cierto se puede imputar al señor mas cuando vulnera la ley

no debemos defender siempre en todo lugar sin excusas el estado de derecho le parece un buen ejercicio de pedagogía democrática decir o venir a decir
que es mejor no aplicar la ley en determinadas circunstancias gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko

por precisar lo que uno ha dicho y lo que no ha dicho usted me ha hecho preguntas en relación con afirmaciones que yo no he pronunciado en ningún momento me preguntaba

pero bueno mire como estamos en el terreno de la pedagogía democrática es bueno recordar en qué consiste

a las que salí a responder mire este es un precepto que habilita al gobierno central a intervenir políticamente una comunidad autónoma

forzando a sus

o adoptándolas por su cuenta al margen y con independencia de lo que opinen y de lo que piensen esos representantes legítimos o esos gobernantes legítimos este precepto contiene un mecanismo que casi de manera unánime la doctrina iuspublicista ha considerado

extremo excepcional es la última ratio fíjese se ha llegado a decir que es el más explosivo de los artículos de la constitución y lo ha dicho nada menos que cruz villalón

presidente durante años del tribunal constitucional y actual consejero de estado por elección

incluso en esa misma época en la que yo hice esa declaración dijo que él personalmente no es partidario de aplicar este precepto por tanto en los últimos cuarenta años

han activado este mecanismo ninguno ninguno ni los de ucd

todos comparten con la doctrina que es un mecanismo excepcional extremo última ratio e incluso como decía cruz villalón el más explosivo de los artículos de la constitución

no estoy solo en la calificación de este precepto como muy excepcional y como yo otros muchos recomiendan la adopción de medidas alternativas

se negocie se dialogue y se tomen iniciativas políticas y no medidas jurídicas de este tipo que hombre una intervención de una comunidad autónoma es una medida jurídica francamente traumática

sí gracias señor erkoreka es una medida excepcional evidentemente que tiene que aplicarse ante situaciones excepcionales yo creo que lo que realmente es explosivo es incumplir la ley

incumplir la ley y por lo tanto lo que yo creo que tiene que hacer cualquier representante político también usted es defender

y por lo tanto me parece que es un ejercicio negativo de pedagogía democrática venir a decir que determinados artículos de la constitución española no tienen que aplicarse qué hacemos si el gobierno de cataluña incumple la ley porque a mí esto sí que me preocupa como ciudadano de un país que se llama españa evidentemente me afecta y me incumbe qué hacemos si el gobierno de cataluña incumple la legalidad vigente nos mantenemos de brazos cruzados

detenemos el funcionamiento del estado de derecho lo ponemos en pause qué hacemos si el parlamento de cataluña declara unilateralmente la independencia

qué es lo que tenemos que hacer evidentemente los problemas políticos se resuelven dialogando y hablando evidentemente sí una cosa es el diálogo también es cierto y otra cosa es el chantaje

siempre pero ante una situación en la que pueda surgir el hecho cierto de que haya una comunidad autónoma concreta que decida vulnerar la ley

defender cualquier representante político y también los nuestros y el gobierno vasco es que tiene que cumplirse la legalidad vigente por eso no comparto que usted considere que sea una medida jurídica traumática una medida jurídica que está incorporada perfectamente en la constitución española

de corazón la posibilidad que me ofrece para seguir haciendo pedagogía política empecemos por las precisiones

artículo no se tenga que aplicar he dicho que a mí juicio no se dan los presupuesto habilitantes que contempla

para que se proceda en los términos en los que se habilita el gobierno central sencillamente para mí no es pertinente en este momento utilizar este artículo no digo que no se tenga que aplicar

pero ya que le veo a usted muy implicado con el cumplimiento de la legalidad ya que comparte conmigo la necesidad de cumplir la ley le voy a pedir un favor usted que hace proclamas sistemáticas en defensa de la exigencia del

incorpore a las leyes que han de ser objeto de cumplimiento la ley orgánica

no requiere de condición de ningún tipo ahí sí que se contemplan competencias que tenían que haber sido transferidas hace muchísimo tiempo a la comunidad autónoma y que los gobiernos sucesivos

no sé por qué nunca le he oído exigir al gobierno central que cumpla esa ley

por favor hágalo también pida que se cumpla el estatuto de guernica que es también ley orgánica y en vigor desde hace casi cuarenta años

lo lleva en su vocación y en la definición ese día veintitrés de septiembre al que usted alude

y además de todo eso que usted hace referencia afirmó de manera clara meridiana y contundente

especialmente con las pymes de este país fue una parte central y muy centrada de su discurso quedó clara en su intervención la vocación

y de trabajo con las empresas tractoras de este país sectores clave y estratégicos eso sí de formas y formatos diferentes y le recuerdo además que kutxabank sigue participando y tiene vocación de permanencia junto con las diputaciones forales y el propio gobierno vasco

por tanto resumiendo preocupación en estos momentos respecto a lo que usted pregunta ninguna eskerrik asko tapia andrea

por haber estado en esa reunión de cebek porque al menos bueno usted fue testigo de que

ante el mundo empresarial cuando desde esta cámara se le reclama algún representante de kutxabank nos dicen que con nosotros no quieren saber nada es que parece que ahí es donde se cuecen

a ellos se les deben explicaciones a los representantes públicos parece que kutxabank no le debe ninguna

y eso nos obliga a estar muy atentos con todos los pasos que se dan guk uste dugu ezin dugula onartu etekina maximizatzea epe laburrean kutxabanken

sabemos que kutxabank es un banco pero sus propietarios son las fundaciones bancarias que son herederas y deben ser continuadoras del espíritu fundacional de las cajas

vamos a tener una actitud absolutamente vigilante con respecto a los pasos que pueda dar

la defensa del tejido productivo propio mediante la facilitación del acceso al crédito pero también mediante el control

clave de kutxabank me alegro que se haya ratificado que eso sea así pero ya es cierto que a día de hoy se está dando un proceso de desinversión y que se han anunciado nuevas desinversiones y por tanto creo que es motivo de atención prioritaria o debería de ser para este gobierno

controlar y atender a que ese proceso realmente no ponga en peligro la unión de esas empresas con el país guk ez dugu esaten inoiz ezin dela

apustu estrategikoak defendatu behar dira a nosotros no nos importaría que se abandonaran inversiones

con el tejido productivo vasco es importante estar encima de este proceso de desinversión para ver qué se vende y que no y que lo que se venda no sea algo que sea estratégico y también a quién se vende

socios y no fondos que van buscando la especulación y el negocio a corto plazo

puede garantizar unas entradas de capital pero luego puede suponer que quién está controlando empresas importantes para el tejido vasco no tenga ninguna unión con este país y lo único que quiera es beneficio a corto plazo

donde por vender a unos fondos de inversión esos fondos han llevado una política antilaboral han destruido empleo

en la medida que kutxabank desinvierta en determinadas participaciones de interés estratégico

en la medida que son fundaciones con grandes patrimonios y financieramente sanas podrían tomar esas participaciones y de esa manera la presencia del grupo kutxabank en ese tipo de empresa de nivel estratégico se mantendría

reafirmando su vocación de pyme o de atención a las pymes de

su participación y su aportación en inversiones ha crecido en más de un sesenta por ciento respecto del año pasado y eso también ayuda

de forma constante sean una realidad por tanto kutxabank como lo decía el propio presidente sigue absolutamente involucrada y comprometida

egoera oso larria iruditzen zaigu ochenta y tres mil pertsona

llevan más de dos años sin empleo personas que corren un gran riesgo de cronificarse en esa situación

a pasar su vida en el paro y por lo tanto caer en la pobreza y en la exclusión social todavía es más preocupante la evolución el desarrollo que se está dando

que hace un año que llevan más de dos años sin empleo

y paradas de larga duración han aumentado en un año más de un dieciséis por ciento y si nos remitimos al dos mil ocho el dato es escalofriante de doce mil trescientos personas paradas de larga duración se ha pasado

veces más hoy más del cincuenta por ciento de personas que están en el paro en araba gipuzkoa y bizkaia son parados y paradas de larga

entre ellas muchas personas mayores de cuarenta y cinco años y esta situación solo la podemos calificar de dramática drama bat da

mismo año la comisión europea ha propuesto orientaciones

las medidas adecuadas para los desempleados de larga duración para que ellos vuelvan a conseguir empleo no es por lo tanto un problema que solo nos afecta a nosotros aunque mal de muchos no es consuelo de tontos

la recomendación de la comisión europea está dirigida a que se ofrezca a estas personas un plan concreto personalizado para determinar sus necesidades su potencial

lo que la comisión llama un acuerdo de integración laboral bueno esa recomendación con todas nuestras limitaciones de buenas prácticas que la comisión recomienda

algún tiempo no con el éxito que nosotros quisiéramos más del cincuenta por ciento del total de las personas inscritas en lanbide han sido convocadas

modificar para actualizar sus datos personales formativos laborales y mantener con ellos entrevistas de cara a valorar su empleabilidad yo ya sé que esto no es suficiente

un empleo y un empleo de calidad en dos mil catorce y durante estos meses del dos mil quince

en marcha servicios de orientación especializada para colectivos con especiales dificultades de inserción entre los cuales se encuentran ciertamente ellos nosotros podemos contratar como ha dicho usted señora arrondo pero fundamentalmente la contratación está fuera del ámbito público entendiendo que en esta situación se encuentran

por parte de lanbide en un trabajo lo más individualizado posible para conocer detalladamente su cualificación

que llevan no ya dos años en el desempleo sino incluso aquellas personas que dentro de los últimos dieciocho meses han trabajado periodos inferiores a doce meses

es fundamental para optimizar incrementar sus competencias y poder facilitar recursos formativos ajustados a su necesidad nosotros podemos orientar

y ya lo dije en la comisión y usted estaba presente que no estamos satisfechos con los datos de intermediación en lanbide estamos trabajando seriamente

realmente en nuestros referentes para que los niveles de intermediación

a niveles razonables todavía no lo hemos conseguido las personas desempleadas de larga duración reciben tratamientos personalizados tratamos de identificar todos los recursos y todas las necesidades que tienen para iniciar lo que se denomina un acuerdo personal de empleo el plan que

ayudas a la búsqueda de empleo formación complementaria así como por supuesto si lo necesitan ayudas para la solicitud de la renta de garantía de ingresos al mismo tiempo gracias también al acuerdo de colaboración suscrito entre lanbide y más de ciento cincuenta ayuntamientos en convenios de inclusión activa al menos las personas muchas de ellas son derivadas a servicios sociales municipales para

distintos ámbitos de la administración en la orientación y seguimiento de estas personas no es más que el inicio de políticas que permiten

continuidad y coherencia del servicio ofrecido digo que no es más que el inicio porque realmente lo que nosotros lo que usted señora arrondo nos pide y nosotros nos pedimos a nosotros mismos no es ni orientación ni formación sino es empleo

nuevo impulso para euskadi nuestros ejes de actuación un primer pilar la innovación oso luzea

en el año dos mil quince las convocatorias de ayudas locales desarrolladas y dotadas con veinte millónes de euros bueno

también podían haber sido dos tienen establecidos como colectivos prioritarios las contrataciones realizadas tanto por las empresas como por las entidades para aquellos trabajadores de los que estamos hablando con mayor vulnerabilidad entre

los que llevan más tiempo en situación de desempleo entiendo que no tenemos que esperar a actuar en esta línea como yo creo que se puede observar

a la que se refiere señora arrondo sino que además para nosotros y nosotras el concepto de desempleado o desempleada de larga duración es

presidenta y buenos días de nuevo señor consejero señora consejera señorías el proyecto de ley de cooperativas bueno el anteproyecto de ley de cooperativas de euskadi se encuentra en la actualidad en fase de debate según las

no será según irekia hasta el treinta y uno de diciembre la conclusión del debate

y el veintiocho de febrero de dos mil dieciséis el borrador se encontrará en fase de conclusiones

por el consejo de gobierno el correspondiente anteproyecto para enviar al parlamento

si viene después de febrero es imposible conociendo los trámites parlamentarios de una ley tan complicada de una ley tan compleja

no dan para que la referida ley pueda aprobarse en esta legislatura y por ello solicitamos al señor consejero de empleo y políticas sociales que nos conteste por favor qué cuál es el motivo de que el motivo retrase de tal manera uno de los proyectos

decir al señor aburto en su momento cuando explicó su plan de actuación

la referencia la expresión más emblemática de la economía social en nuestro país

cierto hay una necesidad de revisar de reformular de hacer una serie de cuestiones en relación con la ley de mil novecientos noventa y tres que fue una ley ejemplar pero que ahora

razones de sistematicidad de necesidad es decir si esta ley viene

es que las comparecencias el trámite de enmiendas el estudio del proyecto de ley va a ser imposible y es una ley

del calendario legislativo del gobierno que está a medias por no decir a cuartos

sobre la mesa pero espero alguna explicación del señor consejero eskerrik asko barrio jauna erantzuteko toña jauna zurea da hitza

sailburua me alegro mucho señor barrio se lo digo de verdad que nos apremie para que esta ley pueda aprobarse antes de acabarse la legislatura

no será porque no hemos tratado de hacer lo que estaba en nuestras manos y si no ha salido antes ha sido porque los agentes especialmente el mundo cooperativo

durante todo este tiempo tiempo y tiempo y tiempo porque algunas dudas tenían de que las cosas no se fuesen haciendo como ellos querían que se hicieran por otro lado usted sabe que para hacer un proyecto de ley pues los tramites qué le voy a contar que no sepa y no quiero

pero también tengo que decir que si todos tratamos de tener la celeridad que usted manifiesta no significa por lo tanto que vamos a agotar los plazos y en ese sentido

la labor de información comunicación que podemos hacer entre todos para facilitar la tarea de tramitación de esta ley podemos hacer realmente que sea posible

dos mil dieciséis y por lo tanto antes de que acabe la legislatura ese es el deseo de este gobierno por supuesto eskerrik asko toña jauna

pero para eso hay que actuar con rapidez y con celeridad señor consejero vuelvo a decir si bien el proyecto de ley como proyecto de ley después de febrero va a ser

porque ya es un trabajo interno el que falta yo conozco el borrador y está ahí el borrador prácticamente se puede decir que está listo para ser debatido parlamentariamente estamos viendo

adecuaciones a la normativa europea estamos viendo cuáles son los procesos que hemos visto

habido un periodo de reflexión el sector ya sabemos

que tienen sus pequeñas dificultades pero por qué si la buena noticia es que va a regenerarse se va a ver va a ser bueno para las cooperativas va a ser bueno para todas para las grandes y para las pequeñas

mecanismos de rigor mecanismos de transparencia que hemos visto en algunos procesos desde luego cooperativos

y eso ustedes ya lo tienen madurado ya lo tienen trabajado

decir hay que ser valientes señor toña en relación con estas cuestiones porque esas cuestiones van a ayudar van a ayudar a lo que queremos todos

cooperativas más dinámicas más adecuadas a la normativa europea

en las líneas directrices de la modificación refundir integrar clarificar revisar

señor barrio en las primeras reuniones que tuvimos fueron precisamente con este mundo en la que se nos pidió más tiempo

por lo menos desde que entré de consejero hemos tratado de acelerar hemos

la memoria económica la memoria de impacto que aborda motivación objetivo y análisis jurídico del contenido del impacto empresarial y la orden de aprobación previa de la propuesta de norma y su texto ya lo hemos entregado manifestamos

ojalá ojalá realmente seamos capaces en trámite parlamentario de aprobar esta ley porque efectivamente mejora

las dudas que tenía el sector y lo que creo sinceramente que el sector quiere es que el anteproyecto fundamentalmente que nosotros hemos mandado se respete razonablemente por este parlamento

tengo que reconocer que ha habido ciertos temores del sector cooperativo fundamentalmente en relación con alguno de los artículos porque tienen algún

en el trámite parlamentario pues pudiera no quedar como ellos entienden que pudieran quedar algunos artículos espero que los grupos parlamentarios seamos todos estemos

mundo cooperativo siga siendo el mundo cooperativo vasco referente mundial y referente del saber hacer

ehuneko hirurogeita hamazazpia igo egin da entre dos mil ocho y dos mil catorce

aumentaron un uno coma uno por ciento mientras que los del treinta por ciento menos acomodado bajaron un cuatro por ciento

en un trece coma cuarenta por ciento eta egoera honetan susperraldiaren adierazle izan beharko lukeen foru

tenemos que empezar a pensar en una revisión consensuada de nuestro sistema fiscal

bidea porque señorías el veinte por ciento de la población vasca que cuenta con mayores ingresos dispone de rentas cuatro coma veinte

este dato en el dos mil doce era del tres coma siete por ciento es decir la brecha se agranda

lo único que se les ocurre es modificar el impuesto sobre la riqueza y las grandes fortunas con la excusa

de apuntalar proyectos y fomentar y ayudar a los emprendedores y hacer atractivo el territorio según palabras del diputado de hacienda de gipuzkoa excusas he dicho y he dicho sí bien

que va a primar los criterios técnicos en política fiscal frase hueca donde las hayas sus palabras no se sustentan en datos y marcan una dirección

beneficiar a aquellos que no quieren aportar al desarrollo del país lo que realmente les corresponde en definitiva las presiones de adegi han empezado a dar sus frutos y lo que nos vendrá hau ahal da benetan progresiboagoa

y progresivo que a algunos nos prometieron pues permítanme que lo dude

una y mil veces que no existen recortes en temas básico como la salud la sanidad o las políticas sociales

la realidad es que actualmente el sistema que tenemos dista mucho de ser un sistema pleno

y esto esto es consecuencia directa de un sistema fiscal errático poco ambicioso y desnortado desnortado en todos los sentidos ya que los niveles de presión fiscal tanto de araba como de bizkaia como de gipuzkoa se sitúan de los del estado español los países bálticos o los países del este cuyos sistemas de bienestar no se caracterizan por ser ejemplares y muy lejos en cambio

como dinamarca o suecia y desnortado porque en vez de avanzar en la tributación sobre el capital la riqueza o el patrimonio improductivo sigue fiándolo todo a una única carta las rentas del trabajo y el consumo egoera honetan diru bilketan benetako arazoa

zerga batzuenganako eskumenak izan ez ditugulako gure zerga guztiak kontrolatzen miren si tenemos en cuenta el peso de los diferentes impuestos

sobre el noventa y cinco por ciento de los impuestos directos y sobre el cinco por ciento de los indirectos en general

de decisión sobre el cincuenta por ciento de lo que recaudan eta hau muga bat da ere eta adibide sinple batekin argi geratzen da

el tema es que este gobierno es responsable de la gran mayoría de las políticas que sustentan o deberían de sustentar un buen estado de bienestar y parece que

no se preocupa cómo va a alimentar esas políticas porque me habla todo el rato del producto interior bruto de los sectores de que el empleo ha ido a mejor de que la deuda empresarial ha bajado

no he dicho que no he dicho hay datos macroeconómicos que son positivos otra cosa es que los tengamos que poner en su entorno

menor por la caída de precios porque el volumen de productos vascos enviados a los países en desarrollo

sí gracias presidenta este humilde servidor público tramitó una pregunta parlamentaria

había dejado de producir y emitir el debate periódico que durante la pasada legislatura se realizaba con los portavoces de las formaciones políticas con representación en esta cámara

la directora general del ente niega que se hayan suprimido los debates pero los datos que ella misma aporta contradicen esa respuesta únicamente se produjo un debate de ese tipo el día diecinueve de diciembre de dos mil doce es decir cuando aún no había cambiado la estructura del ente recién celebradas las elecciones autonómicas desde entonces ni ningún solo debate entre los portavoces parlamentarios

los otros datos que aporta se refieren a presencia de representantes parlamentarios en dos programas concretos que no cumplen el formato de debate de portavoces tal y como se desarrollo

es evidente por lo tanto que la actual dirección de e i te be ha borrado de la programación de la televisión pública el debate entre los portavoces en un intento de

de las fuerzas políticas con representación en este parlamento por todo ello se interpela la consejera para conocer las razones por las que se ha decidido suprimir en etb los debates entre los portavoces parlamentarios por cierto es curioso que a quien lleva denunciando desde hace meses que se han suprimido los debates

uno no se le invita que es lo que pudimos ver hace aproximadamente tres semanas llevamos tres años pidiendo que haya debates entre los portavoces parlamentarios finalmente la televisión pública

convocar y desarrollar un debate entre distintas fuerzas políticas y resulta que a upyd se le deja fuera está claro que a este gobierno no le ha gustado nunca el debate y por eso ordenó a etb que

parlamentarios está claro en nuestra opinión que el partido nacionalista vasco tiene pánico

y a verse acorralado por el resto de la oposición por cierto una pregunta directa dio el pnv orden directa a e i te be de suspender esos debates dio orden directa

pero seguramente ustedes saben más que yo el pnv ordeno suspender los debates entre los portavoces parlamentarios en la televisión pública según se me dice sí aunque usted evidentemente tendrá que decir que no esta es una más de las

una línea de actuación guiada por el sectarismo y la falta de pluralidad política por el favoritismo hacia el gobierno y el partido que lo sustenta es decir el partido nacionalista vasco

de los nacionalistas por promocionar y fomentar la presencia mayoritaria de opinadores y tertulianos de una sola tendencia ideológica por la exclusión y la marginación

básicas de funcionamiento del ente público desde que la señora iturbe fue nombrada directora general de e i te be y con esta interpelación volvemos a abundar en la misma idea

proteger consciente y deliberadamente al gobierno y al partido nacionalista vasco no es una actuación basada en criterios profesionales sino al contrario es una decisión política que se toma para proteger nacionalista vasco los principios básicos de profesionalidad independencia veracidad calidad e imparcialidad que deben guiar e i te be están siendo

encargado de colocar a e i te be en lo más bajo del escalón en cuanto a credibilidad fiabilidad o veracidad y

política de e i te be y al gobierno vasco upyd en su día presentó una propuesta para modificar el sistema de elección del director o directora

se debatió en octubre de dos mil trece fue una propuesta

iniciativa para poner en marcha una ponencia que impulsara cambios en la ley del tribunal vasco de cuentas públicas se votó en contra se rechazó un año después se abre paso la posibilidad de que se modifique esa ley nosotros en todo caso seguiremos insistiendo pero

y que se guie por criterios de independencia veracidad neutralidad objetividad e imparcialidad no le interesa al partido nacionalista vasco y puesto que e i te be está

toma la decisión de suprimir esos debates entre los portavoces parlamentarios en la televisión en fin este capítulo de la supresión de los debates en etb no es más que uno más que uno más de una trayectoria iniciada esta legislatura

y sectaria señora consejera en fin se le interpela para conocer las razones por las que se ha decidido suprimir en etb los debates entre los portavoces

que puedan confrontar diferentes puntos de vista que se invite a la reflexión en relación a temas de máxima actualidad e interés

un magazine informativo con debates entrevistas y reportajes sobre aquello que la actualidad vaya demandando un programa en el que tienen cabida los representantes parlamentarios

también importantes en nuestra actualidad informativa sin ir más lejos el pasado dieciséis de septiembre

fue el tema central del debate minuto a minuto en su estreno en el debate tomaron parte andoni ortuzar hasier arraiz idoia mendia

de mayor actualidad una iniciativa que deja en entredicho las acusaciones que usted ha vertido sobre e i te be

su supuesto intento de rehuir el debate político en las cadenas televisivas

ya que se complementa con la información que genera de manera continua esta cámara usted sabe perfectamente que la actividad parlamentaria tanto de plenos como de las comisiones

criterio que corresponde a los editores y periodistas está presente

además quincenalmente e te be dos conecta en directo con las sesiones de control al gobierno

a la ciudadanía la posibilidad de seguir de cerca control político que la oposición realiza al ejecutivo

agertzearen aldeko apustua la oferta de e i te be se distingue del resto de los medios por su carácter de servicio público en un contexto mediático de máxima competencia

se caracteriza por ser mayoritaria generalista sostenible y responsable

mayoritario como de nicho y equilibrando la creatividad con el marco de valores que propicien la cohesión social maneiro jauna eskaintzen oreka lortu ahal izateko

sí gracias presidenta vamos a ver señora consejera se ha suspendido el

darse en etb un debate entre los portavoces parlamentarios se ha suspendido

se ha suspendido se mantiene o no se mantiene no se mantiene por lo tanto hay una decisión de la nueva dirección de e i te be para que no se produzcan

entre los portavoces parlamentarios de eso es de lo que estoy hablando de debates televisados entre los portavoces

y en castellano si se organizan otro tipo de debates a mí me parece estupendamente incluso aunque a mí no se me invite cuanto más debate mejor si es en euskera me parece perfecto

de un formato específico portavoces parlamentarios y en castellano antes se hacía y ahora no se hace y según se dice es como consecuencia de que al partido nacionalista vasco ese formato le incomodaba porque se evidenciaba su soledad

de e i te be de suspender ese formato yo no sé si se dio orden de suspender ese formato lo que sí digo es que ese formato ya no existe y les agradezco a usted y a la dirección general de e i te be que me entrevisten tantas veces como quieran en euskera

políticos otros partidos políticos extraparlamentarios no tengo ningún problema me parece estupendamente yo lo que reclamo es un formato específico que antes

debate un debate que se llevó a cabo el día diecinueve de diciembre del año dos mil doce es decir con la dirección anterior e incluso ha llegado a citar

del año dos mil doce es decir de la pasada legislatura si echamos la vista a lo que ha ocurrido en esta legislatura queda perfectamente claro que ese formato ha sido suspendido por qué porque le incomoda al partido

en minoría porque no le gusta que el resto de partidos políticos le critiquen y me parece muy bien que e i te be informe de todo lo que ocurre en este parlamento me parece perfecto

donde participen determinados representantes públicos es estupendo perfecto pero es el formato anterior debate televisado en castellano entre los diferentes portavoces parlamentarios después de estar reclamando durante dos años y medio este formato ustedes organizan un debate y dejan fuera como

a upyd por cierto debate después del cual se produjo una mesa de no debate

los mismos argumentos eso no es pluralidad política y me parece también muy bien que haya debates todas las semanas en la radio estupendo

una vez al mes perfecto estupendo pero no hablo tampoco de la radio hablo que yo le señalo un formato que antes existía y que ahora pues no existe y evidentemente presentaremos la moción correspondiente para que la nueva dirección tome nota de lo que este parlamento llegado el momento y si hay acuerdo pues pueda exigirle más pluralidad

más debate político si el partido nacionalista vasco está en minoría

que se defienda como pueda pero que no de orden a la dirección de suspender determinados debates en determinados formatos gracias

señor maneiro la dirección toma las decisiones con total autonomía nadie ha llamado para pedir un cambio

usted llama pluralidad a reproducir los debates que se dan en esta casa por qué debería e i te be reproducir el formato utilizado en la legislatura anterior

cuando hay otros muchos temas programas etcétera que demanda la audiencia de etb más aún cuando contamos con otros canales específicos que ofrecen dicho seguimiento

que emite en directo todos los debates parlamentarios que se producen en los plenos ordinarios y en la mayoría de las comisiones irekia es una herramienta del gobierno vasco un canal de comunicación abierto a toda la ciudadanía

del gobierno y también de la actividad parlamentaria lehenengo txandan esan dudan bezala

la directora general presentó al consejo de administración las líneas generales de programación estas fueron favorablemente acogidas con el voto positivo de todos los miembros del consejo incluidos los representantes de los partidos políticos con representación en esta cámara posteriormente el dos de septiembre la directora general presentó

que a usted tanto le preocupa el consejo de administración conoce perfectamente al igual que también usted lo hace que etb cuenta en la actualidad con dos espacios de entrevistas tertulias y debate azpimarra en etb uno

espacios en mi opinión perfectamente válidos para fomentar el debate entorno a temas de actualidad

en definitiva señor maneiro considero que la cobertura informativa y la oferta de debates en torno al ámbito político y parlamentario está en la actualidad perfectamente cubierta en e i te be

que goza en general de escasa presencia en los medios de comunicación de

pero ha de saber que en estas cuestiones es importante conocer la representatividad y la relevancia política que otorga la propia ciudadanía amaitzeko

zurea da hitza sí muchas gracias señora presidenta formularé la pregunta desde mi escaño con su permiso

queremos que usted convoque las becas de colaboración las va a convocar definitivamente este año

non unibertsitateak eta ikerbasquek parte hartuko duten la segunda conclusión a la que hemos llegado es la necesidad de fijar bien el objetivo de este programa y de forma ordenada no se trata como indica usted en su pregunta de ofrecer a los universitarios una oportunidad de conexión con el mundo laboral

que cumplimenta su formación y que además pueden tener reflejo en el suplemento europeo al título por ejemplo están las practicas externas extracurriculares tanto fuera como en la propia universidad

o programas como lehen aukera se trata de formar en investigación de incentivar la vocación investigadora y de retener el talento en grupos de investigación excelentes de euskadi ese es el objetivo

señora uriarte usted va a pasar a la historia como aquella consejera que tuvo muy mal encuentro con las becas

la única comunidad autónoma que tiene competencia en becas y usted ha quitado las becas de idiomas de lenguas para

las becas de excelencia y ahora las becas de colaboración cuando señora se está pensando en un recurso

hasta que ese nuevo recurso esté en funcionamiento había un recurso que funcionaba y estaba funcionando de maravilla de maravilla la prueba está en que todas las administraciones llevaban muchos años funcionando se podían haber hecho

pero funcionaba de maravilla durante años y permitía que aquellos alumnos que estaban en el último curso del segundo ciclo de su carrera

acceder mediante esa beca a lo que era una real en investigación en grupos de investigación o en centros docentes que usted no los ha mencionado ahora usted me dice yo voy a hacer un cambio

quiero hacerlo efectivamente y específicamente para la investigación pero dónde está su recurso dónde está

y he de decirle que los demandantes de las becas de colaboración son personas reales algunas de ellas están hoy aquí caso de alumno vasco que acude a una universidad española y que quiere acceder a una beca de colaboración con buenas notas con posibilidades de conseguirla

pero sí sabe de otros compañeros que estudiando fuera de euskadi tienen posibilidad de acudir a las becas de colaboración del resto del sistema educativo español

en la universidad vasca esto es claramente una desigualdad si usted quiere hacer todas las investigaciones que quiera

y establecer las alternativas que quiera hágalo haga juegos en el alambre pero tráigalos cuando usted lo tenga tenga ya verdaderamente corpus completo la criatura formada y realmente entonces puede decir traigo algo mejor y puedo sustituir el recurso de otra manera señora usted está generando una discriminación clarísima entre los alumnos vascos

una competencia específica que tiene el país vasco las becas señora usted tiene que aplicarse con las becas porque precisamente las becas son aquellas que reparan las desigualdades de origen de los alumnos y en eso usted

y no lo vamos a olvidar no vamos a renunciar a esto vamos a seguir demandando las becas de colaboración en este parlamento

kolaborazio bekei buruz como le venia diciendo en mi anterior intervención este gobierno venia trabajando en el lanzamiento en un programa piloto

eguerdi on guztioi vaya por delante la posición de los socialistas vascos en relación con e i te be defendemos una radio televisión publica de calidad reflejo de la pluralidad de esta sociedad que atienda nuestra realidad sociolingüística

y que genere productos que se puedan consumir en todos los nuevos formatos y por el mayor numere de agentes y quiero recordar que esta reflexión la veníamos trayendo de forma insistente a esta tribuna

o un agravio no es nuestra intención agraviar a nadie no se trata de la crítica por la crítica

creemos que hay razones más que suficientes para hacerlo estamos ante una ofensiva legítima de empresas privadas para captar audiencia a través de canales de pago una campaña que ya está afectando

son las retrasmisiones de fútbol y baloncesto y los derechos de las mismas han sido adquiridos por esas empresas privadas a precios inalcanzables

así que debemos enfrentarnos a una posición de merma de audiencia pero no podemos aceptar que esta situación se acepte con resignación los responsables de los medios de comunicación saben por donde se mueven los mercados y los gustos de la audiencia lo deben saber y hace tiempo que tenemos indicadores claros de por donde van los gustos de los ciudadanos sabemos

hoy en euskadi se llevan detrás ni más ni menos que casi el cuarenta por ciento del total de la audiencia

reaccionaron con una batería de decisiones empresariales la primera de gran calado la concentración de canales a partir de ahí definieron sus estrategias unas con ofertas más populares otras con ofertas de productos audiovisuales más elaborados unos y otros diversificando a su publico en otros canales del mismo grupo

pero etb no ha reaccionado vemos y con mucha preocupación que gran parte de sus expuestas para remontar en audiencias son corta pega

y que tienen cierto éxito entre los vascos pero sin una apuesta integral propia hay excepciones cierto y somos plenamente conscientes de las dificultades del mercado sobre todo cuando como compartimos con la dirección hay que fortalecer la propuesta de euskera pero en general

a falta de un año de mandato en una mera declaración de intenciones para cubrir la legislatura pero que renuncia a pensar en el futuro y creemos que asumir esta realidad es el paso previo a encontrar soluciones del análisis de la realidad de los retos vendrán las propuestas para afrontar el futuro con éxito

ya sabíamos que la mayoría estábamos engancha dos a la comunicación

medios digitales en el que ver la televisión a la carta

pero se sumó la generalización de teléfonos inteligentes que alejan aún más a los ciudadanos del sofá

y esta realidad es masiva en una generación entera

sabiendo todo esto sabiendo el auge de los canales en abierto de las tdt sabiendo que iban a llegar nuevas empresas de pago qué

de e i te be seguir como siempre con la práctica de la prueba error en cada nuevo programa con alguna excepción y no podemos seguir como siempre por nuestra parte los socialistas

la defensa a ultranza de lo que hay ha querido contaminar nuestra intención

es uno de nuestros retos modernizar el servicio público de radio televisión

y cuando todo apunta a mermas no solo de audiencia sino de ingresos por publicidad

no por más subvención del gobierno para tapar los agujeros sino mediante la generación de productos

de nuestros cuatro canales televisivos los socialistas no gestionamos e i te be no tenemos ninguna vinculación con su dirección

en todos los ámbitos pero no estamos aquí solo para criticar queremos aportar porque defendemos el servicio público desde esa voluntad queremos preguntarle a la señora consejera

porque es la única manera de encontrarnos cara a cara con usted señora consejera lo demás las preguntas por escrito son respuestas de la dirección que ya conocemos y aunque se empeñe en repetirlo nosotros requerimos

señora consejera usted tiene responsabilidades importantes con respecto a e i te be su departamento tiene que velar en primer lugar porque el ente público cumpla con los objetivos que le asigna la ley

de e i te be ante la evidencia de que el público vasco como el de otras partes está variando sus preferencias y formas de consumo le interpelo le hago la siguiente interpelación

junto con la dirección de e i te be para afrontar la situación creada

que en el primer lustro de la década anterior el mercado de la televisión constaba de siete cadenas e te be uno e te be dos televisión española uno la dos telecinco

que era codificado en total seis cadenas en abierto

sin embargo en dos mil cinco zapatero decidió remover el sector de la televisión por una cuestión que socialmente se entendió como argucia política en concreto concedió a mediapro una licencia de televisión analógica

una cadena quizá más afín al partido socialista que el grupo prisa

como contra medida se permitió a canal plus pasar a régimen abierto a través de la creación de cuatro por supuesto el resto de televisiones protestaron puesto que la decisión de zapatero suponía una mayor fragmentación de la tarta publicitaria

además el tiempo puso en cuestión la viabilidad de estos proyectos de ampliación de canales abiertos ya que ambas cadenas fueron posteriormente absorbidas por los gigantes atresmedia y mediaset

que sorprendentemente se encuentran en la actualidad en la mejor situación empresarial de su historia por desgracia la cadena de decisiones más o menos interesadas en el mercado televisivo español tampoco terminó ahí el apagón analógico del dos mil nueve

hecho que permitió sobrepasar de cuarenta canales en abierto es de sobra conocido que el gobierno central volvió a favorecer a los grandes grupos

sin haber convocado concurso alguno para ello y mientras tanto las televisiones públicas autonómicas tenían que vérselas para convivir en un entorno en el que cada vez habría más competidores que al mismo tiempo eran cada vez más fuertes horri guztiari krisi ekonomiaren eragina gehitu behar diogu

se especializará cada vez más en la marca euskadi se centrará cada vez más en los ámbitos propios y más cercanos

se diferenciará en el enfoque editorial propio de servicio público y de preservación de un punto de vista propio dedicará además especial atención a los espacios informativos

también se realizará un esfuerzo adicional por la especialización en franjas de público infantil y juvenil donde se ha detectado un nicho importante de mercado

también ofrecerá contenidos sociales y deportivos en euskera mediante etb hd asimismo etb se convertirá en

estamos viviendo en euskadi un momento glorioso para el cine vasco el mejor reconocimiento a todo esfuerzo realizado no ya por las instituciones sino por directores escritores actores músicos fotógrafos técnicos y productores ha florecido de la mano de la película loreak

a un ingente trabajo realizado con pasión ilusión y enorme profesionalidad

una obra a la que el gobierno vasco ha ofrecido todo su apoyo y colaboración como lo ha hecho con otras muchas producciones

que todo el esfuerzo ha valido la pena al igual que vale la pena el esfuerzo que hacemos para ayudar a escritores a productores de obras de danza guionistas compositores musicales etcétera nuestra labor la labor de las administraciones debe ser de ofrecer nuestro apoyo para que todo el talento existente en este ámbito pueda materializarse con éxito

intentando que me responda a los boletines que le planteo lo he intentado por diferentes vías pero tengo que reconocer

la mayor parte de su intervención la ha dedicado hacer un relato de lo que ha ocurrido desde décadas atrás para luego dar cuatro o cinco pinceladas que ya las conocemos porque la dirección se ha manifestado en esa línea de que usted aquí nos ha dicho pero yo

el respeto lo que nosotros queremos saber es si usted su departamento el gobierno están preocupados con la marcha de e i te be con los retos que tiene

de afrontar la situación de dar directrices a la dirección de e i te be y de colaborar con ella para dar solución a los problemas que planean sobre el ente

la opinión de la dirección la conocemos la respetamos no la compartimos está dando pocos frutos todo lo que usted nos ha dicho realmente

la dirección no cuenta con nuestra confianza es evidente porque pensamos que no está respondiendo adecuadamente

de creación del ente señora consejera como usted bien sabe somos críticos

de e i te be también reconocemos los aciertos que tiene

a criterios de imparcialidad pluralidad independencia y de interés general mire le voy a poner un ejemplo que usted ha mencionado usted ha mencionado aquí

dos días en ese programa se dio una clara evidencia de cómo se gestionan

de programas por e i te be por etb en este caso concreto es un programa el minuto a minuto que

después de unas cortas entrevistas a diferentes personas una mesa de cuatro personas un dato cuatro hombres por cierto debatieron sobre el tema propuesto uno de los invitados

otro monedero defendió que por motivos tácticos mejor era no hablar claramente de izquierda el parlamentario matute que está integrado en una coalición

es una coalición heterogénea que va desde el centro independentista hasta su grupo de extrema izquierda pasando

que precisamente no se define como persona de izquierda y que trató de poner

en ese programa faltaba precisamente la izquierda representada por el partido más antiguo de euskadi la corriente que representa

como es la social democracia en este caso el interés general existía pero la falta de pluralidad y de rigor desbarató el programa y esto es un ejemplo de cómo se actúa

de sumar audiencias a e i te be pero también los socialistas estamos seriamente preocupados por la gestión empresarial del equipo de dirección ejemplos hay muchos en el terreno de la gestión de recursos humanos

ahora nos preocupamos por la competencia que tiene esa dirección para abordar el reto que hoy planteamos mire señora consejera si quiere ayudar a mejorar

ante los retos planteados implíquese en ello resuelva el contrato programa que ya lleva cuatro años sin renovar

inste al grupo parlamentario que le apoya a que no ponga palos en la rueda para activar la comisión especial de reflexión sobre el futuro de e i te be que nosotros consideramos puede ser una herramienta idónea para abordar esta cuestión nosotros como bien sabe tenemos nuestra propuesta de modelo

y queremos compartirla con todos tenemos propuestas para hablar de la adaptación a la nueva realidad del mundo audiovisual tenemos ideas para operar cambios en el terreno normativo e incluso en la elección y carácter del consejo de administración

el debate con seriedad muchas gracias eskerrik asko

por tanto señor unzalu considero que e i te be ya está haciendo una gran labor para manejarse en ese entorno de adversidad e te be

resúmenes amplios de la jornada liguera y de retransmisiones de segunda división de fútbol

como puede suponer la dirección de e i te be estaría encantada de poder seguir contando con esa oferta sin embargo se han desorbitado los precios de las pujas de deporte hasta cifras inalcanzables por etb además movistar plus ha demostrado su interés en acaparar todos los contenidos de pago en exclusiva se podría conseguir el partido abierto en primera división pujado por televisión española

bai handiekin erresuma batua frantzia eta alemaniarekin baita txikiekin ere por poner un ejemplo la legislación estatal deja una amplia capacidad de decisión a los operadores para distribuir o no distribuir canales de televisión de este modo nos encontramos con que movistar plus únicamente distribuye e te be uno y e te be dos pero no distribuye ni etb hd ni etb hiru ni etb lau esto se traduce en algo tan absurdo que como

puede ir en detrimento de la difusión de las cadenas de etb así mismo el decreto

este que fue denunciado en marzo de dos mil quince una situación harto complicada que e i te be está gestionando a pesar de todas las complicaciones de manera adecuada

e i te be centrará sus esfuerzos en el desarrollo de las ocho líneas estratégicas establecidas en el plan estratégico dos mil trece dos mil dieciséis que usted conoce como miembro del consejo de administración del mismo entre otros aspectos habla de la necesidad de ser líderes en información y actualidad para que el grupo e i te be sea la principal referencia alternativa de reforzar la audiencia en euskara

el necesario equilibrio presupuestario en un contexto de menores recursos entre otros

y en todo caso tal y como usted ha dicho ya que se ha creado una comisión a iniciativa de su grupo parlamentario con objeto de analizar y dar respuesta a todas estas cuestiones le diré que espero

por el bien de e i te be y de nuestra sociedad en general eskerrik asko uriarte andrea

empezó usted preguntando por la que opinión me merecía

dos jóvenes por posible delito de atentado a la autoridad y desorden publico

antes de llegar con la pregunta al estrado a cambiado su formulación y hablaba entonces de

falso testimonio ahora acusa a presuntos intenciones del departamento vamos variando paulatinamente usted sabe que le voy a responder a la pregunta exactamente que me ha hecho cuál es mi opinión respecto a la emisión

falso testimonio usted sabe que el código penal en el epígrafe de delitos contra la administración de justicia establece con claridad cuales son

que constituye un delito en este caso en el caso del que estamos hablando igual que en cualquier otro si la magistrada juez hubiera estimado que hubo falso testimonio lo habría reflejado en la sentencia y habría abierto diligencias o al menos

se tomaran las medidas oportunas o se depuraran responsabilidades no ha ocurrido ni lo uno

pero usted ya ha abierto juicio usted ha abierto juicio y además

detrás de esto de una sentencia que no es firme y según hemos podido saber está recurrida por el ministerio fiscal ante la audiencia provincial su único objetivo una vez más

del juicio paralelo y poner en entredicho una vez más a la
ertzaintza y al departamento de seguridad eskerrik asko

a la ertzaintza sino las declaraciones falsa que esta emite ante

que estamos viendo ahora un ertzaina concreto y en la sentencia se dice que sus declaraciones no encajan con las imágenes que se pueden ver en ese video y además

el despliegue de en qué casos no está encajando yo no digo falso testimonio en un sentido penal si quiere se puede decir que

imputación fraudulenta o si se quiere en términos políticos también como sostengo lo que realizó es

no encajan con las imágenes que la defensa pudo presentar yo no sé si la defensa

porque en este video además que se pudo presentar en juicio

era absolutamente pacífica que mostró una actitud de desobediencia pasiva y que no le producía e este ertzaintza ni a ningún otro ningún tipo de daños sin embargo

vuelvo a decir miente sobre el origen de la herida que presuntamente tiene en la rodilla pregunto por qué tenía un interés personal

por venganza toleran este tipo de comportamientos interpondrán algún tipo de medida disciplinaría

yo creo que verifica una voluntad del departamento de seguridad de dar una falsa imagen de lo que suponen realmente las herri harresiak de crear una ficción sobre ella de quién participa en ellas ejercen violencia de que lesionan a ertzaintzas a ertzainak

penal esta ficción política en el atentado a la autoridad una realidad que es falsa una verdadera ficción que ha sido desvelada ahora por este tribunal ya que la realidad es que las herri harresiak no son fuentes de violencia si no que son objeto de ella

consejera y es que no encuentre enemigos en las herri harresiak

impulsan que busque las razones que impulsan estos actos de protesta y que tal vez cuando las encuentre entonces podemos ver cómo superarlas

consejos vendo que para mí no tengo aplíqueselo y me ratifico en todo lo que le he dicho anteriormente

también es una persona con derechos a la presunción de inocencia y por tanto

hubiera estimado que hubo falso testimonio su obligación es haber actuado y haberlo reflejado en la sentencia haber abierto diligencias haber advertido al departamento también

su objetivo es únicamente uno nuevamente poner el foco

juzgar lo siento mucho pero es que los delitos se juzgan se juzgan en los tribunales

paralelos y menos cuando las sentencias todavía no son firmes

yo no entiendo este acoso permanente por su parte hacia las personas que trabajan en el departamento de seguridad y hacia las persona que trabajan en la ertzaintza que también
el derecho de presunción de inocencia lo mismo que las personas que intervenían en los harresi que usted hacía referencia eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia

señor consejero de salud transcurridos ocho meses de ejecución presupuestaria y según podemos visualizar en el informe de la situación presupuestaria de agosto de dos mil quince vemos que muchas partidas relacionadas con infraestructuras

y queremos desde el grupo popular saber cuál es la razón

todas esas partidas relacionadas con inversiones sanitarias muy importantes que estaban previstas en nuestra comunidad autónoma eskerrik asko garrido

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok eguerdi on guztioi señora garrido le agradeceré me dé ese informe de ejecución presupuestaria que usted ha leído

dezaket zuk emandako datu horiek ez dutela zerikusirik errealitatearekin la ejecución de las inversiones sanitarias

se van desarrollando dentro de la normalidad y cumpliendo los trámites que el marco normativo la contratación administrativa y el resto de disposiciones legales

es nuestra voluntad y obligación ser totalmente escrupulosos en el cumplimiento de los trámites legales establecidos dicho esto le informo

a treinta de septiembre de dos mil quince ascienden al setenta y uno por ciento del presupuesto de inversiones concretamente señora garrido se han contabilizado treinta y tres coma siete millónes de euros

pero señor consejero donde están esos treinta y tres millónes a parte de en su imaginación si tenemos aquí la relación a las inversiones sanitarias previstas estaba previsto ejecutar treinta y siete coma cinco millónes de euros y solo se han

esto es la información oficial que ustedes remiten al parlamento vasco

esta es la información por lo tanto no falte a la verdad bueno vemos que este gobierno falta a la verdad

demasiadas declaraciones de intenciones demasiada autopropaganda demasiada autocomplacencia pero mire señor consejero los datos sus datos

sistemáticamente se empeñan en negar en una materia tan importante como las inversiones sanitarias ustedes nada de nada de treinta y siete

ejecutados lo que le he dicho muchas partidas importantes cero pero es que cero en lo que tiene que ver con la disposición de gasto es decir no en dispuesto ni el gasto por lo tanto no sé de dónde se saca esos treinta y

los habrá soñado esta noche imagino que preparando la pregunta de hoy por eso le pregunto yo señor consejero van a ejecutar alguna de las partidas previstas

en esta hojita que son los presupuestos que ustedes aprobaron que son los suyos los de su gobierno que aprobaron con el apoyo del partido socialista y le digo esto si tiene previsto

porque es que encima hemos conocido que ustedes van a tener que ajustar estos presupuestos viendo que se han equivocado y han reconocido que se han equivocado en las previsiones de crecimiento económico pero es que ustedes ya nos hablaban al principio de la legislatura usted y recordará que yo le hice una pregunta en este pleno de control qué pasaba con las inversiones

las inversiones que ya hemos visto que están sin ejecutar y usted decía

para inversiones en el departamento de salud por lo tanto señor consejero queremos saber por qué este gobierno no está ejecutando estas partidas queremos transparencia que nos diga la verdad y basta de excusas

pleno de política general cuando encima hizo referencia

durante el último año es decir metió las del año dos mil catorce quiere decirnos qué van a hacer con las inversiones previstas ya de una vez esas inversiones que están a cero

a la ejecución presupuestaria en el mes de agosto qué van a hacer estos tres meses encima viendo que ustedes van a tener que realizar ajustes porque ustedes mismos han reconocido que van a tener que hacerlos

en las previsiones que tenían de crecimiento en este año eskerrik asko garrido andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

no debió seguir atentamente la intervención del lehendakari el lehendakari en el pleno de política general refirió las inversiones

escuche el lehendakari se refirió a las inversiones ejecutadas desde el último pleno de política general

cualquiera que siga mínimamente la actividad del departamento de salud se hubiera dado cuenta de que los datos ofrecidos que le hizo ofrecer usted a la señora quiroga estaban errados los equipamientos y las obras en los sistemas sanitarios no se hacen sin dinero y osakidetza no es una excepción

se inaugurará la semana que viene el centro de zestoa se han hecho este año parte de las obras

se ha hecho parte del centro de salud de miribilla se ha hecho parte

y se ha licitado el instituto de biocruces sin hablarle de los equipamientos usted cree que esto lo hago yo con seiscientos cincuenta y dos mil euros que le hizo decir a la señora quiroga usted cree

mire señora garrido apúntelo y busque a alguien que se lo explique en la bancada

el noventa y cinco por ciento de las obras previstas

se lo voy a repetir el noventa y cinco por ciento de las obras previstas señora garrido

se ha licitado un nueve por ciento más que el ejercicio anterior y se han adjudicado el sesenta por ciento yo ya le entiendo que a usted le gustaría que las cosas vayan mal pero esto